arratsalde on guztioi el pasado diciembre la comisión europea impuso una multa de aproximadamente mil setecientos millónes de euros a cinco grandes bancos

citibank y a un intermediario financiero rp martin

la razón de tal multa es simple durante años habían manipulado los índices euribor tibor y libor

recordemos que el euribor es el índice europeo de oferta interbancaria es un índice de referencia publicado diariamente que indica el tipo interés promedio al que las entidades financieras ofrecen a prestar dinero en el mercado interbancario del euro

es un diario de la tasa de referencia en base a los tipos de interés al que los bancos ofrecen a prestar sin garantías los fondos a otros bancos en el japón el libor

a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista o mercado interbancario británico

así lo denominó almunia yo añadiría el calificativo de criminal estos bancos actuaban como un cártel criminal ya que utilizaban

y en última instancia contra los derechos e intereses de la ciudadanía la multa que la comisión europea les impuso es la más alta impuesta jamás en la unión europea

ha robado gracias a esa actividad mafiosa recordemos que pactaban el precio del dinero pactaban el precio de prestar dinero

al final son aquellos mismos que defienden ese mundo de libre competencia los que se ven denunciados por prácticas contra la competencia vaya paradoja

estos bancos utilizaron información confidencial y funcionaron y repito las palabras del vicepresidente de la comisión y responsable competencia joaquín almunia como un cártel y yo volveré a incluirlo el calificativo de criminal ya que las consecuencias derivadas sobre las familias

han sido desastrosas generando auténticos dramas sociales no olvidemos por ejemplo que el cálculo de los intereses de las hipotecas se realizan en relación al euribor

cuántas personas han pagado intereses por encima de lo que deberían haber hecho por culpa de este cártel criminal cuántas personas no han podido pagar los intereses impuestos y se han visto desahuciadas

esto es lo que se pretende denunciar y solucionar hoy aquí la multa que se les impone se centró en que manipulaban estos índices interbancarios y que no solo se beneficiaban económicamente de ello sino también del intercambio entre entidades de información de debería ser confidencial praktika

ese es el sector del que estamos hablando posiblemente el sector económico más fuerte y que no solo se ha visto resentido su poder durante el periodo de crisis que ellos mismo generaron

en euskal herria tenemos aún una posibilidad de articular kutxabank como ese banco público

no venderlo y perder con ello el mayor activo financiero que tenemos para salir de la crisis nada nos hace pensar que con la multa impuesta a estas entidades financieras vayamos hacia una situación mejor más bien todo lo contrario esta noticia no deja de ser una noticia excepcional

sino más bien por lo poco habitual que es la multa no tiene consecuencias lesivas para los bancos ya que por la manipulación en los índices ganaron millónes de millónes de euros

las consecuencias de su comportamiento no tendrá consecuencias reales en su día a día y no las tiene por una razón porque nadie quiere entrar a regular ese sector

y no entrar a solucionar el problema de raíz se prefiere multar de manera simbólica a poner trabas a la realización de esas prácticas esperemos que no sea anecdótico

del sector financiero ya que en definitiva es un sector estratégico argi eta garbi esan behar dugu gehienetan boterearen egon diren agindariek nahiago izan dutela

benetako neurriak hartu ordez hoy lo que presentamos pretende ser un inicio un paso hacia delante

aceptamos que es un paso modesto pero es lo máximo a lo que hemos podido llegar

ya que la ciudadanía no es tonta y la publicidad negativa que van a recibir estos bancos y aquellos que hayan participado en chanchullos similares

quizá más que la multa de la propia comisión europea ponemos en valor el esfuerzo realizado por todos los grupos firmantes y por aquellos grupos que quizá voten a favor de esta enmienda transaccionada paso a leerles la enmienda en su totalidad que hemos alcanzado y el acuerdo el parlamento vasco rechaza y denuncia todas las prácticas fraudulentas que el sistema financiero haya realizado

segundo punto el parlamento vasco apoya la sanción impuesta por la comisión europea a cinco bancos y al intermediario financiero rp martin y las investigaciones que mantiene abiertas sobre hsbc credit agricole y jp morgan

al objeto de castigar e impedir las prácticas bancarias fraudulentas el tercero el parlamento vasco solicita del gobierno vasco la certificación sobre si existen relaciones financieras con los bancos multados por la comisión europea cuarto el parlamento vasco insta a kontsumobide a realizar un listado de las reclamaciones recibidas en kontsumobide en relación con las prácticas

a este parlamento y a articular con las asociaciones de consumidores un sistema de asesoramiento sobre los diferentes productos financieros que permita antes de la contratación de los mismos el conocimiento exacto de lo que se va a adquirir y los beneficios y riesgos a los que se enfrenta el cliente

a través de todos los canales disponibles para ello incluyendo los medios de comunicación públicos para que de esta manera todas las personas que hayan sufrido situaciones derivadas de este acto puedan conocer el procedimiento a realizar de cara a presentar una reclamación y que conforme se actúa en procesos de este tipo esta puede ser tramitada en el instituto vasco de consumo cinco puntos que son un inicio para una reflexión aún mayor sobre la necesidad de poner encima de la mesa la responsabilidad del sector financiero en el expolio social que se lleva a cabo hoy en día

cinco puntos que deberemos desarrollar en el futuro pero que hoy queremos ponerlos en valor ya que no son muchas las ocasiones en las que podemos decir que de alguna manera

el poder político se enfrenta al poder financiero y adopta medidas para su control en definitiva un buen acuerdo eskerrik asko lópez de munain jauna

presidenta señorías la iniciativa que trae hoy aquí bildu nos permite hacer una alerta sobre lo que se ha relatado sobre lo que está sucediendo en parte del sistema bancario nos permite también hacer tomar alguna medida para

a quienes puedan padecer prácticas fraudulentas por parte del sistema bancario y también nos permite hacer alguna reflexión en un tiempo en el que a consecuencia de la política bancaria de la política financiera

financiero nuestro país y otros países del sur de europa estamos viviendo y sufriendo una situación económica y social lamentable y dramática que tiene su origen como he dicho

en ese sistema financiero llama la atención en este caso que una serie de bancos que han estado durante muchos años

de esas prácticas fraudulentas engañando a millónes de ciudadanos terminen

apoyamos una sanción que consideramos que era necesaria hacerla pero que sin embargo tiene un coste relativamente pequeño y relativamente pequeño tanto en sí mismo como si lo comparamos

de la unión europea ha habido sanciones en el sector de los fabricantes de televisores ha habido sanciones en el sector de fabricantes de automóviles donde las multas han sido cuatro y cinco veces mayores que las de estos bancos en situaciones económicas probablemente no comparables incluso dentro de lo que es el sistema financiero y dentro del sistema económicoh hoy hay expedientes también a otros sectores

expedientes que están ahí que se están tramitando que no sabemos cuáles son sus resultados pero que de alguna forma están siendo investigados porque también

de haber utilizado toda esta situación económica de estos últimos diez doce años para haber hecho cosas que se escapan a lo que

las reglas de juego en un sistema que está reglado es evidente que el coste de algunas actuaciones fraudulentas no es igual cuando se hace hacia un sector económico

hemos tenido que sufrir durante todos estos años seguimos sufriendo

una deuda pública exagerada una deuda privada exagerada el haber gastado más de lo que se tenía

mantener esa deuda pública unas exigencias de déficit absolutamente inasumibles

de especuladores a los que nadie les ha puesto freno hasta pocos meses y a partir de ahí se ha empezado a ver la mejoría en el coste del dinero en el coste de la prima de riesgo pero mientras una serie

aquellos que recalentaron la economía aquellos que daban crédito no solo al que lo pedía sino también al que no lo pedía y que se olvidaron de establecer los controles suficientes

y funcionara todos ellos resulta que en este momento con todos los estragos que han hecho a la situación económica tienen

sanciones se les abren expedientes que efectivamente

tienen su importancia pero que quedan muy lejos del sufrimiento y del coste que sin embargo sus políticas equivocadas han producido sobre la sociedad esta sociedad la sociedad española las sociedades

por tener un determinado endeudamiento como consecuencia de su política financiera hemos pagado en empleo en empresas en coberturas sociales

en infraestructuras en oportunidades de inversión una situación de la que algún día se podrá arrojar más luz de quién ha sido los auténticos responsables

sin embargo aquí con una multa fácil de pagar con una multa

de una cuantía pequeña estos bancos que han estado en esta actitud económica y política durante tanto tiempo prácticamente han resuelto su situación

algunos han hecho un juego casi perfecto se han dedicado a hacer fraude luego lo han contado al contarlo se les ha sacado

cuando ya se les ha echado encima el sistema de sanción se han dedicado a colaborar y gracias a esa colaboración también han encontrado

en la penalización que por ese fraude tenían dela unión europea

tienen una enorme facilidad para recalentar la economía para especular con el dinero para hacer fraude con el dinero después para o autodenunciarse sino para ser colaborador y finalmente para que entre unas cosas y otras

lo último que queda de esas sanciones tenga una cuantía y tenga una dimensión de bastante limitación por eso yo creo que

no es solo para recordar que esto está ocurriendo en europa

que están bajo investigación sino también para llamar la atención a la ciudadanía

hay que tomar medidas y también a las instituciones y a los poderes públicos es necesario que el gobierno que

los mecanismos que tiene el gobierno a su servicio puedan ayudar a los consumidores

de productos bancarios puedan ayudar a saber cuáles son sus derechos puedan ayudara a saber en caso de que hayan sido víctimas

qué es lo que pueden hacer incluso que pueda existir una labor preventiva en el futuro que aquellas personas que van a tomar un producto financiero

puedan encontrar a través del sistema de protección a los consumidores

puedan encontrar esa posibilidad de asesoramiento para que

lo hagan con plena seguridad sabiendo cuál es el alcance de él

hemos apoyado y hemos participado en la confección de una enmienda transaccional que si no hay ninguna sorpresa

por unanimidad porque yo creo que el contenido de esa iniciativa de esa transaccional es óptimo para que pueda ser planteado por unanimidad y para que también este parlamento de alguna forma lance un mensaje a la ciudadanía de que las

fraudulentas hay que perseguirlas hay que perseguirlas

pero también hay que prevenirlas y que este parlamento está

y que en la medida en que estos abusos suceden más allá de cuál sea nuestro nivel de competencia tenemos todo el nivel de incumbencia

eta baita aberastasuna sortzeko ere a fin de garantizar la integridad de los índices de referencia

que permitan controlar los conflictos de intereses y mantener la confianza en que exista tal integridad

febrero se aprobó una directiva en el parlamento europeo que los estados miembros deberán transponer a su legislación

de la entrada en vigor de la misma es decir en el dos mil dieciséis se han establecido en esta directiva unas normas mínimas en relación con la definición de las infracciones penales cometidas bere helburua da bermatzea batasuneko

hubiera sido aplicable a la elaboración de índices de referencia a la aportación de datos de cálculo a ese respecto y el uso de índices de referencia en la unión europea algo muy importante y necesario a juicio de nuestro grupo parlamentario y esperamos que también pueda aprobarse en breve berriro diogu

todas las prácticas fraudulentas que el sistema financiero haya realizado somos rotundos en esta afirmación esan denez

gracias presidenta me parece bastante razonable la transaccional que han firmado los diferentes grupos nada más gracias eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta yo también voy a ser

yo creo que estamos todos de acuerdo que evidentemente nadie está de acuerdo en que le timen ni los bancos

y por lo tanto apoyaremos la transaccional que se ha hecho pero sí quiero matizar algunas cosas que se han dicho o sea en la sanción que se pone a estos cinco bancos se pone porque el sistema funciona

bildu ha puesto una denuncia en ningún sitio y nos ha salvado o este parlamento hoy haciendo esto

es decir lo que demuestra es que el sistema funciona que la comisión europea por una vez por lo menos ha funcionado y que sanciona

el parlamento vasco apoya la sanción impuesta y en su propia iniciativa dice que es la mayor que se ha puesto entonces tampoco entiendo muy bien algunos discursos que he escuchado aquí ha funcionado la comisión y para una vez que funciona vamos a felicitarle porque es evidente que ha sido la comisión europea la que ha descubierto el fraude y la que ha puesto la sanción a los bancos no somos

nada de esto y no es cierto que nadie quiera regular esta materia yo si todos están de acuerdo en lo que se está diciendo aquí espero que sigan apoyando

que la unión bancaria y que haya un único regulador bancario en toda europa en la unión europea que es banco central europea y que todas las entidades bancarias

parámetros a las mismas obligaciones yo sé que esto no es muy nacionalista porque se está hablando de ceder competencias a otra institución pero si todos estamos de acuerdo en que hay que regularlo porque si se dan cuentan ustedes los cinco bancos

hay dos ingleses un francés es decir cinco bancos de un mismo país no lo hubieran podido hacer porque el órgano regulador de ese

para dotar de más medios a la unión europea y a la comisión es que cuanto antes la unión bancaria en europa se haga y yo oyéndoles a todos ustedes

no es que aquí vayamos a solucionar hoy nada es precisamente la unión europea como ya ha dicho la representante del partido nacionalista vasco la que ya aprobó una directiva y está aprobando un reglamento para homogeneizar

para que en todos los países se pueda sancionar penalmente por estos hechos que evidentemente se puede pensar que son delictivos o no pero si no figuran en el código penal

pues aquí yo lo que sí quiero es felicitar aunque sea por una vez en la historia de este parlamento a la comisión europea

la iniciativa que presento en nombre del grupo popular hace referencia al sector lácteo y concretamente a los posibles efectos que para este sector tendrá la supresión de cuota láctea en abril de dos mil quince treinta años

y dentro de un año desaparecerá este cambio tan importante para un sector básico como es el sector lácteo

y la pregunta que se hacen y que nos hacemos

si son suficientes las nuevas disposiciones de la política agraria común para evitar las posibles crisis de mercado

del sector lácteo son varias las reuniones a nivel europeo estatal y autonómico que se han realizado sobre este asunto porque la preocupación es importante la nueva pac política agraria común

pero se pone de manifiesto y se duda de que puedan ser suficientes

me refiero a los contratos entre productores y a las nuevas competencias que tienen

también ofrece instrumentos de planificación y gestión del mercado

en españa somos deficitarios en producción de leche producimos seis coma cinco millónes de toneladas que no cubren la demanda cifrada en nueve millónes de toneladas el sector español y también el de nuestra comunidad autónoma a lo largo de los últimos años ha hecho un gran esfuerzo de mejora

amparado siempre por las administraciones y con el objetivo de ofrecer un producto de calidad y seguridad y buscando su rentabilidad esto no ha estado exento de dificultades en determinados momentos

el sector lácteo español más allá de dos mil quince donde participaron

las conclusiones del posible escenario ante la desaparición de las cuotas lácteas viene a decir que inicialmente en españa puede representar una oportunidad porque la producción no cubre la demanda interna y esto

en un escenario de firmeza de la demanda puede ser favorable pero inmediato no estará exento de riesgos si no se abordan estrategias empresariales tendentes a mejora de la competitividad la eficiencia la reducción de costes la diversificación y segmentación en la producción esto que dicho de corrida así de manera muy rápida que justo son cuatro líneas puede suponer la bajada de persianas para muchas explotaciones que hoy ya están en situación crítica la desaparición de las cuotas según los expertos puede afectar de manera

y modelos de explotación en función de su mayor o menor posibilidad de adaptación además se han identificado riesgos mayores para las explotaciones situadas

siempre hemos tenido en cuenta y muy claro en el país vasco las dificultades que representan las explotaciones que están

de los cauces propios de transporte las dificultades para la

o para el suministro de materias primas en muchas zonas para el grupo popular son preocupantes las tendencias y signos que hacen

por la repercusión que pueda tener en las materias primas de uso básico para la alimentación animal en las explotaciones

importantísimo que además como también hemos repetido muchas veces pero vemos la necesidad de insistir aporta otros muchos valores fija la población en el medio rural mantiene el paisaje las tradiciones

un gran reto que le va a exigir la puesta en marcha de medidas de modernización de adaptación e innovación para minimizar el impacto de esta nueva

la necesidad de disponer de herramientas adicionales especificas para afrontar los problemas que pueden afectar a los márgenes de los productores

desarrollar sobre este asunto españa defenderá que se incluyan medidas adicionales en la red de seguridad destinada al sector lácteo en la nueva pac desde el grupo popular entendemos necesario que en nuestra comunidad

lácteas a nuestro sector lácteo y de esta manera poder plantear medidas ajustadas a sus necesidades para apoyar y mantener la producción

por qué no si tenemos capacidad a la iniciativa que nosotros hemos presentado en la que pedíamos como les decía el estudio profundo de la afección que puede tener el sector lácteo en nuestra comunidad autónoma y

hacer un listado de medidas que pueden fortalecer nuestro sector lácteo se han hecho enmiendas de los grupos y hemos llegado a una enmienda de transacción entre el grupo nacionalistas vascos el grupo socialista a los que yo quiero agradecer

a un acuerdo y que yo creo que la enmienda de transacción que es

en esta materia desde la unión europea el gobierno de españa y la comunidad autónoma vasca

elaboren un informe en el plazo de tres meses que contenga la evaluación especifica sobre los efectos de la supresión del régimen de cotas lácteas

y las medidas necesarias para apoyar y mantener la producción láctea en nuestra comunidad también desde el parlamento instamos al gobierno de españa a que en la definición de las condiciones para ser beneficiario de los pagos acoplados para el sector de vacuno de leche

de enero incorpore medidas autorizadas por la unión europea porque en este momento

que apoyen prioritariamente a los productores de leche de zonas desfavorecidas y de montaña así como que establezcan acciones de apoyo a la innovación y la calidad

a apoyar a las regiones en las que se produzcan situaciones de dificultad en la producción de leche especialmente en las zonas de montaña con dificultades añadidas y en

así como a revisar la situación como muy tarde en el dos mil diecisiete una evaluación intermedia que está prevista pero

recalcarla y poner de manifiesto promoviendo y estableciendo medidas y ayudas especificas

caiga de forma significativa y este es el texto que ponemos a votación de los miembros de esta cámara nada más muchas gracias

sí gracias presidenta buenas tardes bueno siendo ya el último punto

tratamos hoy lo que pretende en definitiva es que haya una evaluación y unas medidas ante los posibles efectos negativos de la supresión de cuotas lácteas que se producirá por la normativa europea

del próximo año del año dos mil quince los socialistas ante esta iniciativa presentamos en su momento una enmienda con tres objetivos

un informe que analizase la desregulación de las cuotas lácteas y que además contuviese medidas específicas compensatorias para el mantenimiento y la viabilidad de la producción láctea

al gobierno de rajoy a promover medidas que incluyan indemnizaciones que compensen a los productores por las inversiones a realizar para adaptarse al nuevo régimen y también a establecer acciones de apoyo para promover la calidad y la innovación así como planes de ayuda para los ganaderos y ganaderas más jóvenes

pleno uso de las herramientas estatales disponibles para apoyar y mantener la producción de leche en euskadi evitando un impacto económico social y medioambiental negativo y había un tercer objetivo para esa enmienda que era instar a las instituciones europeas a apoyar

a garantizar en definitiva un buen funcionamiento del mercado allá donde la mayor parte de la producción

y sobre todo que respaldase a los pequeños productores revisando la situación como decía antes la señora lópez de ocáriz

en el año dos mil diecisiete para poder establecer medidas a tiempo si se demuestra que la producción láctea pues caía de forma significativa bien

de los socialistas esto proviene de es una mínima parte de una resolución que el once de diciembre del año dos mil trece

europeo y fundamentalmente para intentar mantener la producción láctea en zonas de montaña en zonas desfavorecidas y en zonas ultraperiféricas

de cuotas lácteas los socialistas vascos hemos

varias iniciativas ante el gobierno vasco tanto con respecto a las ayudas al sector lácteo como sobre los efectos económicos de la desaparición del sistema

que el cincuenta y seis por ciento de las explotaciones y el doce coma cinco por ciento de la cuota

que implica la supresión de cuotas lácteas porque el sector de la leche el sector lácteo es un sector sensible que ha atravesado y atraviesa especiales dificultades porque ha padecido crisis de precios costes de producción que han puesto en cuestión su viabilidad durante varios años

va a atravesar dentro de un año un período crítico al verse afectadas muchas explotaciones lácteas del país vasco y más aún si tenemos en cuenta que en marzo

existían en euskadi quinientos veintitrés explotaciones que tenían cuota láctea y que el gobierno vasco prevé para el año dos mil quince que existan cuatrocientos treinta y seis por lo tanto desaparecerán habrá disminución de explotaciones

de toda la producción agraria en euskadi y de las explotaciones que tienen cuota láctea en cuanto a su ubicación de un total de quinientos veintitrés explotaciones diez se ubicaban en zonas

once explotaciones pertenecían a zonas desfavorecidas y no de montaña y sin embargo cuatrocientos noventa y dos el gran paquete se situaba en zonas desfavorecidas de montaña

de cuotas tomando como eje principal el régimen de pago base que pudiera fijarse en el marco de la reforma de la política agraria común y que el ministerio de agricultura todavía no había cerrado y también se estaban estudiando las diversas medidas que se pudieran incorporar en el plan de desarrollo rural en el nuevo plan de desarrollo rural porque es difícil cuantificar la dimensión que este nuevo sistema de no cuotas puede provocar respecto a la desaparición de las explotaciones en euskadi

de este hecho un nuevo digamos sistema le añadimos o tenemos en cuenta otros factores también importantes para el sector lácteo como la edad media de los titulares de explotaciones o la evolución de los costes de alimentación del ganado el comportamiento de los precios de la leche las inversiones necesarias para seguir produciendo estos productos

un difícil acceso a la financiación pues podemos fácilmente concluir que el panorama que está por llegar no está para muchas alegrías o al menos sienta bastante preocupación

importante y significativo que el propio parlamento europeo a finales del año pasado

más ayudas y medidas a distintos niveles gubernativos e institucionales para apoyar a los productores del sector lácteo a afrontar ese fin de las cuotas lácteas es verdad que es una resolución no vinculante pero sí es significativa si tenemos en cuenta que

para aquellas explotaciones que se sitúan en zonas de montaña en zonas desfavorecidas y al considerar que además estas explotaciones tendrán escasas posibilidades de beneficiarse

por eso se solicita a los estados miembros a las regiones a que hagan pleno uso de las herramientas disponibles para apoyar y mantener la producción de leche en estas regiones y así evitar

negativo las medidas que deben incluir indemnizaciones para compensar a los productores por esas inversiones que necesitarían realizar y adaptarse al nuevo régimen

apoyos que promuevan la calidad y la innovación y ayudas sobre todo para algo que está siempre latente en el mundo agrario y es la posibilidad del relevo generacional el parlamento europeo también solicita la movilización de la comisión europea

más complejas y también garantizar un buen funcionamiento del mercado en aquellos países dónde la mayor parte de su producción procede de esas pequeñas explotaciones

para analizar las especificidades y problemáticas de este sector decidiese el nueve de octubre la inclusión del sector vacuno de leche con carácter prioritario en esa concesión de ayudas acopladas a día de hoy son cuatrocientos sesenta y cuatro explotaciones con vacuno de leche en euskadi que perciben ayudas de algún tipo

cuatrocientos cuarenta perciben pagos acoplados por vacuno de leche y con los nuevos criterios del ministerio de agricultura sobre las condiciones para ser beneficiario de ayudas

y por eso es ahora cuando se hace más necesaria que nunca la existencia de pronunciamientos institucionales y gubernativos también parlamentarios acompañados de acciones de gestión realmente es lo que importa lo que se va a llevar a la práctica

en todos los niveles competenciales de forma que no se deje al sector lácteo vasco abandonado a su suerte

para paliar y solventar situaciones difíciles y complicadas que seguramente se van a generar estamos satisfechos de la enmienda de transacción a la que hemos podido llegar con la proponente

ha sido un sector de la leche la entrada en la ue supuso un cierto vuelco ya en el ochenta y seis era el veinticuatro por ciento de la producción final agraria y hoy es el quince por ciento si en el ochenta y nueve tenía sesenta y nueve mil cabezas en once mil explotaciones

en dos mil doce se produjeron ciento setenta y cuatro millónes de kilos de leche

en cualquier caso y a pesar de su descenso el valor de la producción anual es de setenta y cuatro millónes de euros

y gestionan dieciocho mil quinientos hectáreas luego es un sector económicamente relevante

luego es un sector concentrado como se ve al observar que se han reducido en los últimos diez años el setenta y seis por ciento

horiek ustea lan horren konplexutasuna eta abar sin ser partidario como aquí se me ha oído varias veces de la cuota preventiva previa a cualquier programación económica no tengo por menos que cuando hablamos de productos agrarios con desequilibrios estructurales en la relación producción consumo defender la imprescindibilidad de crear organizaciones de mercado que los estabilicen

se optó por crear el sistema de restricción de la producción dando una cantidad máxima por país que es lo que se llamó la cuota láctea

es que a veces la semántica nos confunde porque antes hemos oído el paquete de la leche y realmente es el paquete lácteo porque podemos

la cuota láctea estaba prevista inicialmente para cinco años duró la leche hasta el dos mil quince

a pesar de que haya podido tener algunos efectos negativos en lo que

ante la desaparición de la cuota el comité de las regiones de la ue sí ha recomendado realizar una serie de estudios

a la comisión un nuevo proyecto de desarrollo lechero para las zonas de montaña

nosotros estamos básicamente y es lo que nosotros venimos en parte a solicitar a las instituciones y organizaciones agrarias vascas al ministerio español y a las instituciones de la ue

de conocer lo que realmente vaya a ocurrir porque no lo sabemos pero no augura nada bueno en principio si ya cuando suiza abandonó la cuota láctea

tenemos dónde mirar en nuestro caso los datos previsionales ya apuntan a un incremento de la producción del cinco por ciento y un descenso de precios del diez por ciento

lo que pueda ocurrir con el sector lácteo es trascendental para el efecto global de la agricultura en euskadi y puede poner en trance

ya que es un sector tractor y acompañante de múltiples subsectores agrarios e industriales en el fondo se pone en riesgo gran parte del sector agrario y nos llevaría de nuevo a plantear el problema de lo que pueda suponer

produjeron indeseados efectos de desaparición de explotaciones contradictoriamente pero es una realidad la desaparición de las cuotas y lo que suponga de desestabilización de precios puede llegar a ser laminador y provocar mayores descensos de la producción láctea

a las explotaciones menores con inferior cuota y sin lugar a dudas más equilibradoras del territorio la producción láctea en euskadi es un sistema de producción agraria

debe combinar con sistemas de explotación menores eficientes también y vinculados al suelo a la tierra más en un país como el nuestro fundamentalmente de montaña y por tanto con déficits naturales que deben ser compensados euskadiko esnegintza sektorea gai da bere gain hartzeko

para ello se debe aprovechar el cierto caos que puede venir

que llama al caos siempre viene el orden para aparte de medidas de ayuda a las exportaciones reordenar aspectos sectoriales

la puesta en valor de la leche propia y la elaboración de productos transformados en cualquier caso y antes de finalizar que ya lo voy a hacer después de este pestiño quisiera volver a homenajear a frisia y a sus vacas frisonas grandes productoras de leche y que seguramente se verán afectadas

en cualquier caso definitivamente la ocupación del suelo con actividades económicas sostenibles y productoras de alimentos es lo que hará de la marca euskadi algo más coherente sostenible responsable y diversificado porque el abandono del suelo agrario

un fracaso de toda la sociedad muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

el grupo bildu y el resto de la cámara que francamente creo que no hay nada que aproximar sino que son posturas radicalmente opuestas pero si he salido es porque ha hablado usted

porque tal vez para que nos hable de eso podría traer usted algún compañero suyo

fue rápidamente a vender sus cuotas y se embolsó una importantísima cantidad de dinero

de decir lo que tienen que hacer los demás pero que ustedes no la practican y ya le he puesto en otras ocasiones algunos otros ejemplos y es llamativo

de lo que luego son incapaces de practicar incapaces de practicar y tienen ustedes en su seno los mejores ejemplos

mire por favor un poco de respeto que en esta comunidad autónoma nos conocemos todos perfectamente y sabemos qué hace cada uno por lo tanto no sé a quién pretende engañar no sé a quién pretende engañar

cómo son las ganaderías de leche de montaña en austria

viven de las asociaciones que tienen de trabajo para hacer para

viven principalmente de los servicios que prestan a estaciones de esquí no de las ganaderías de montaña que son

una mera estampa del paisaje pero no son

de esta cámara hemos tenido oportunidad de ir parlamentarios y visitar y verlas por lo tanto no nos ponga ese ejemplo porque no tiene nada que ver con las explotaciones que

de producción económica que tengan rentabilidad que además aportan otros valores que ya le he dicho antes la protección del paisaje del medio ambiente es que cómo se lo tenemos que decir creo que es

y que queremos explotaciones que tengan un mínimo de rentabilidad para aquellos que producen puedan vivir del trabajo que realizan de eso hablamos pero ustedes no hablan de eso ustedes no hablan de rentabilidad de qué viven entonces los productores de qué van a vivir si no es productiva si no es rentable su explotación

sí que importa pequeñito chiquitito local hay alguna producción de leche que no sea local toda es local

efectivamente pues claro es que francamente usted vende aquí una historia que no cuadra habrá cuatro que le seguirán pero es que no cuadra no es la estampa de producciones del país vasco no es

por lo tanto difícilmente podemos ponernos de acuerdo porque ustedes fijan más el interés

no de vivir de la recolección de residuos como pretenden ustedes no ese no es nuestro modelo no es por lo tanto señor lazarobaster su modelo primero

no son capaces de aplicarlo y segundo no representa a nada de la comunidad autónoma nada del sector se

es una teoría que no se aplica entonces yo creo que ya se lo hemos dicho bastantes veces en bastantes ocasiones de distintas maneras y usted

que está agotado ya creo que hemos demostrado por activa y por pasiva

no es ni aplicable ni funciona ni es rentable ni tiene ninguna posibilidad en esta comunidad autónoma eskerrik asko

sí gracias presidenta brevemente para aclarar algunas cuestiones que yo creo que han quedado en el aire después de la intervención del representante de euskal herria bildu

el sector lácteo de la unión europea va a funcionar sin un sistema de cuotas lácteas y además se espera que el nuevo escenario provoque perturbaciones en el mercado

del sector lácteo algo habrá que hacer porque

los modelos productivos está bien es muy interesante pero cuando en los foros en los que se analizan esas situaciones se viene a decir que bueno aquí hay de todo como en botica sindicatos y organizaciones agrarias

de producción intensiva y sindicatos y organizaciones agrarias que cuestionan ese

han producido un deterioro irreversible al sector vacuno de leche y que son partidarios de ese modelo productivo pegado a la tierra a quienes la trabajan

hunde al sector productor en pocos años entonces estamos enfrentando dos modelos cuando en realidad el modelo de producción lácteo es variado en euskadi es variado puede haber una mayor digamos concentración de un modelo productivo intensivo pero

que decía usted señor lazarobaster decía claro nadie se ha acordado de los problemas medioambientales no es cierto usted sabe que hemos planteado y además en nuestra enmienda venía cómo

precisamente para poner medidas y acciones que palien los efectos negativos económicos medioambientales y eso lo ponemos negro sobre blanco por lo tanto yo al menos mi grupo no se ha olvidado de la cuestión medioambiental

hacia cuál hacia la soberanía alimentaria esa es la única digamos alternativa que cabe aquí no hay otra posibilidad

hay unos modelos productivos que además llevan a que le modelo de soberanía alimentaria sea el viable y eficaz pues bienvenido sea pónganos el ejemplo e igual es cuestión

pues prácticamente todo está inventado pero es que no hay ningún modelo usted sabe que demuestre al cien por ciento su viabilidad y su eficacia como modelo de producción entonces podemos hacer discursos que suenan muy filosóficos muy

pero cuando llega una enmienda que lo que procura es ser práctica y realista

y simplemente diciendo que es una enmienda que tan solo plantea ayudas cuando es un sector el lácteo que se va a ver enfrentado

que las instituciones no propusiéramos absolutamente ningún compromiso

que palien esos efectos negativos sería una irresponsabilidad por nuestra parte que yo creo que bildu o ha sido un exceso a la hora de hablar seguramente entiendo que no sería esa su intención pero ha sonado muy raro

ayudas no no hay más que ayudas son compromisos gubernativos de acciones y medidas y creo que eso es lo importante gracias eskerrik asko corcuera andrea

realmente yo quiero simplemente congratularme por la transacción a la que hemos llegado el grupo socialista el grupo popular y nosotros

usted ha repartido a todos y no se ha hecho la más mínima autocrítica llevan más de tres años en la diputación de gipuzkoa y ni han criticado

y no han puesto ninguna medida para cambiarlo hacia no se sabe qué modelo

vuelvo a recordar cuidado con la semántica no es lo mismo lácteo que de la leche no es lo mismo ante el sector lácteo hoy por hoy

y lo suyo menos lo suyo es una generalidad lo nuestro es una generalidad con algunas especificidades ya me gustaría a mí para el sector lácteo tener un plan de la leche no lo tenemos porque nos falta información nos falta realidad de lo que va a ocurrir en cuanto la vayamos teniendo

podremos hacer un plan de agricultura de montaña esas son las concreciones lo otro son generalidades muchas gracias eskerrik asko